para reformar la ley que regula el tribunal vasco de cuentas públicas

con motivaciones diferentes es verdad lo que da una idea de los intereses que les han llevado a traerlas al parlamento intereses legítimos evidentemente pero de partido cada uno del suyo y no de transparencia o de evitar puertas giratorias como se esfuerzan en argumentar ambas propuestas plantean una modificación única la eh bildu no busca transparencia busca cuota en el tribunal su cuota

es como si pensaran que siempre iban a tener la misma presencia parlamentaria que hoy tienen la del pp está engarzada en la definición de la cualificación

a vocal del tribunal nos parece más acertado ese acercamiento pero no es desde luego muy acorde con lo que hace en otros organismos públicos en el conjunto de españa

en madrid ni siquiera con mayoría absoluta los socialistas estamos abiertos a abordar la reforma de esta ley y la de todos los organismos que dependen de este parlamento

queremos actualizar todas las instituciones ponerlas al día y no seguir actuando por inercia de normas que hace dos o tres décadas

lo que se no pide sobre todo es eficacia en la gestión en la prestación de servicios

y también en la fiscalización de las cuentas de las distintas administraciones que es la función de este tribunal y con esta filosofía consideramos positiva la revisión del ararteko tal y como reflejamos en las enmiendas que hemos presentado también con esta filosofía hemos planteado revisar el modelo de radio televisión pública despolitizarla abrir a los ciudadanos y convertirla en motor de la industria audiovisual

poner nuestras administraciones en el siglo veintiuno mediante mecanismos de colaboración para ser más eficaces y ganar en igualdad para los vascos

de cómo mejorar el tribunal de cuentas hace poco más de un año este parlamento a iniciativa de mi grupo aprobó la ley de incompatibilidades que regula los conflictos de intereses

en el ejercicio de la política y en el desempeño del cargo público esta ley debe reflejarse en todas las instancias los miembros del tribunal de cuentas también

los socialistas propusimos a dos personas de acreditada experiencia en materia contable y auditora porque creemos que son óptimas para el desempeño de las funciones

del ruido que se quiera generar en este debate no debiera despistarnos de lo esencial la pregunta es a la que se intenta responder los proponentes

de cuotas partidistas como plantea bildu o eludimos el debate sobre las propuestas de este parlamento como plantea el pp nosotros preferimos preguntarnos cómo se puede mejorar el funcionamiento del tribunal cómo evitamos conflictos de intereses

y cómo adaptamos este organismo a las exigencias ciudadanas de este siglo esas son las líneas en las que va a trabajar mi grupo para mejorar unas propuestas de reforma legal muy limitadas fruto más de un impulso de un momento que de una reflexión seria que es lo que hacemos los socialistas cuando traemos reformas legales
a un trámite parlamentario muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

eta hori izango da prestigiatzeko modua sí porque se elimina a todas aquellas personas a todas aquellas bildurena

guztien aurretik no vamos a dejarnos condicionar por las falsedades

que están reivindicando que lo que buscan es la objetividad y la neutralidad cuando solo se han hecho del órgano del tribunal cuando solo se han hecho propuestas precisamente

política cuando están condicionando la participación de sujetos de cualquier persona que hubiera sido por ejemplo beneficiaria de una subvención por parte del gobierno vasco o de cualquier presidente o tesorero por ejemplo

o por ejemplo de funcionarios que hubieran tenido o tengan en activo de responsabilidad o una responsabilidad en relación con gestión inspección o intervención de ingreso o gasto en la administración pública vasca

según las propuestas realizadas sí podríamos estar y no estaríamos sujetos a sospecha como miembros del tribunal vasco de cuentas públicas para terminar quiero decir

que el grupo nacionalistas vascos ha presentado todos tienen una experiencia profesional probada tienen una cualificación académica

los y las mejores para realizar las funciones para las que han sido elegidos hori da guk uste doguna

de confianza no del principio de sospecha que últimamente algunos partidos políticos pretenden instaurar dependiendo de quién es si es el señor josé luis bilbao

que pasó del gobierno vasco al tribunal vasco de cuentas públicas nombrado por eusko alkartasuna está sujeto a ningún principio de sospecha sino al principio de confianza zintzotasuna

honestidad es lo que hace falta y coherencia con los principios para juzgar a lo que todo el mundo hace eskerrik asko eskerrik asko gorospe

ante la intensificación de la mal llamada crisis migratoria surgieron voces de gobernantes políticos y supuestos expertos en el tema asegurando que este no era un problema europeo sino africano o en todo caso de oriente medio la estremecedora imagen de aylan kurdi el niño kurdo sirio y yaciendo inerte en una playa

en grecia conmovió a la opinión pública mundial y puso en relieve

no fue el primero ni será el último que paga con sus vidas la crisis desatada por la desestabilización de un país siria desgraciadamente convertido
en el blanco de siniestros cálculos geopolíticos de estados unidos y de sus aliados isiltasuna mesedez que destruyeron uno de los países más prósperos y estables de la región

estrukturala sustatu zutelarik la responsabilidad de europa es mucho mayor visible e inocultable en el caso del áfrica subsahariana

y saqueó durante siglos al mal llamado continente negro sino las potencias coloniales europeas quiénes

quién organizó los tráficos de esclavos a través del

europeas o es que los colonialistas de hoy creían que podían salirse con la suya y no pagar la cuenta de los crímenes y fechorías de sus antepasados cómo podrían los gobiernos europeos y sus mandatarios decir que la mal llamada crisis migratoria que tantas muertes ha causado y seguirá causando

se ha establecido un reparto de personas refugiadas esas famosas cuotas

personas una miserable cifra que supone el cero coma tres por ciento de su población

más de medio millón de personas han cruzado las fronteras europeas en busca de asilo y cuando recordemos además que países como líbano o siria

más de dos millónes de personas es decir más del veinte por ciento de su población como contrapartida al número de personas establecido por la unión europea para acoger en los países miembros también se ha aprobado una normativa de devoluciones en caliente de devolución cuanto antes de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular

que destaca la convención europea de derechos humanos europar batasunaren migrazio kontrolerako politikak erratuta daude giza eskubideetan

porque bajo la excusa de guerra civil en siria se ha llevado a cabo una agresión pergeñada desde afuera por estados unidos y sus compinches europeos al igual que pasó hace unos años en libia

y respaldados política y diplomáticamente mientras cometen toda clase de desmanes

brotó incontrolable el estado islámico con luz verde para perpetrar horrendos crímenes y destrucción de reliquias históricas porque tuvo que huir del infierno en el que washington y los gobiernos europeos convirtieron a su patria

que supieron poner freno a la expansión militar del estado islámico en sus territorios

disfrazada de ejércitos sirios libres asimilables con lo que fueron los contras nicaragüenses de los años ochenta desde sus bases

a los que los gobiernos de estados unidos llamaban combatientes de la libertad

es tan difícil no reconocer el rostro del fascismo en todo lo que está sucediendo cuando potencias occidentales anuncian el envío de armas a los disidentes sirios de qué está hablando cuando invasores encuentran como amigos del pueblo sirio para reunir fondos millónarios destinados a pagar los sueldos de mercenarios

una vez más estamos viendo como sin ningún pudor estas potencias pretenden entrar en siria llevarla a la guerra con la excusa de luchar contra el terrorismo

renovados contingentes además de refugiadas y refugiados golpeando las puertas de la opulenta europa en ese gran mapa de operaciones de rapiña imperialistas también además del áfrica subsahariana siria o libia las que hemos mencionado no nos olvidamos y tenemos ejemplos en irak afganistán

a las guerras para usurpar territorios y controlar recursos en un proyecto

la mayor acción terrorista de estos tiempos son las invasiones militares que protagoniza la otan con sus hordas mercenarias sobre países indefensos

esta precisamente sería la de retirar sus tropas de los países invadidos y ocupados en lo que va de siglo

tendría que modificar radicalmente su política migratoria y hacerse cargo de su responsabilidad en la crisis actual

esto de los derechos humanos por lo que lo único que aparece en el horizonte europeo es una política de mayor control migratorio de cierre de fronteras de expulsión

o de los sueños fascistas del gobierno israelí de extenderse por todo oriente medio lo que supone

exigiendo protección a los responsables de esta tragedia y no habrá muro que resista tal y como expresaban las compañeras de eh bildu en un artículo de opinión al respecto decir welcome refugees también es gritar

al imperialismo que son la causa de muerte e injusticia fuera y dentro de oriente medio

de la moneda nos ha permitido ver también una sociedad civil organizada una sociedad civil crítica y organizada

bajo esos principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos empujando a muchísimas instituciones a mostrarse favorables a la acogida de un modo digno de las personas refugiadas en este sentido hemos visto múltiples muestras de solidaridad también en esta comunidad autónoma por parte de diferentes

hacer lo mismo en esta institución en la proposición que hoy estamos debatiendo y posteriormente conocimos por medio de los medios de comunicación la actuación del gobierno vasco en relación con las instituciones y con las organizaciones sociales además de la comparecencia del consejero toña en la comisión de derechos humanos

que teníamos en relación a esta cuestión no solo por parte de eh bildu sino por parte trasladadas de manera directa por parte de los ayuntamientos y también tuvo ocasión de trasladarnos cuál es esa planificación que van a llevar a cabo con la ayuda de las organizaciones sociales allí les trasmitimos nuestra disposición a colaborar con la planificación que tenían planteada

les dijimos que estaríamos vigilantes porque hasta ahora era la parte teórica viene la práctica y estaríamos muy vigilantes con estas cuestiones asimismo hablamos de la preocupación porque no se

que el propio consejero también hizo referencia al problema que hubo porque no tuvo previsión

las personas que vengan se van a quedar con nosotras y nosotros en relación

enmienda transaccional que han firmado todos los demás grupos

referencia en mi segunda parte de la intervención pero no quiero finalizar unas más que oportunas palabras de saramago

es inevitable no valdrán alambradas muros ni deportaciones vendrán por millónes europa será conquistada por los hambrientos vienen buscando lo que les robamos no hay retorno para ellos porque proceden de una hambruna de siglos y vienen rastreando el olor de la pitanza el reparto está cada vez más cerca las trompetas

el odio está servido y necesitaremos políticos y políticas que sepan estar a la altura de las circunstancias eskerrik asko eskerrik asko urrea

preparándonos para asumir el problema con la intensidad que corresponda y dentro de nuestras competencias nos hubiera gustado en coherencia con esa

esta se hubiese expresado en el arranque del curso político en el pleno de política general con una declaración institucional hicimos lo que estuvo en nuestra mano

apoyaban esta postura pero no fue posible porque quien hoy trae esta iniciativa prefirió desmarcarse de la mayoría optó por marcar la diferencia antes de procurar la unanimidad

por desgracia en el futuro el apoyo de todos son los propios refugiados los que necesitan el consenso

por eso debemos afrontarlo desde la unidad aunque todos no tengamos el mismo análisis

si bien es cierto que europa y el llamado primer mundo tenemos que asumir responsabilidad en lo ocurrido aunque tengamos diferencias en el tratamiento del problema este no debe ser materia de confrontación

no merecen ser objeto de discusión política exige el respeto de todos los partidos y la necesidad de ponernos de acuerdo el martes mismo el congreso de los diputado nos dio un ejemplo en este sentido

una iniciativa a propuesta del partido socialista el consenso que se obtuvo allí es el que los socialistas nos gustaría que se trasladara a este parlamento vasco

habíamos tenido en este parlamento para ser el primero en pronunciarse si no hubiera sido por la actitud sectaria de algunos pero los socialistas estamos empeñados en ser eficaces y responsables ante esta emergencia que nos disponemos a atender y también

que se presumen en los próximos tiempos porque estamos hablando quizás del mayor problema humanitario social político y a corto plazo económico que afronta nuestra sociedad

está causada por la imposibilidad de vivir en los lugares de origen las personas que vienen de oriente próximo y medio o de áfrica huyen de territorios que pudieron constituir en su momento naciones con un origen lengua religión y costumbres más o menos costumbres

para que sus derechos fueran respetados hoy la situación de guerra con diferentes frentes y actores les hace imposible la vida hace unos días

a un ciudadano alemán que decía que por qué no se quedan en arabia saudita u otros países del golfo pérsico ya que allí tienen el mismo clima la misma lengua y en la mayoría de los casos la misma religión la respuesta es bien sencilla todos estos refugiados y refugiadas

en el sentido de adquirir una ciudadanía que les permita disfrutar de derechos y libertades que le reconozca su condición de ciudadanos por eso los que pueden intentan llegar a europa con la esperanza de que aquí les acojamos y les convirtamos en sujetos de derecho ya sabemos

pero sus deseos de comenzar una nueva vida digna están depositados en nosotros europa tiene que demostrar su grandeza su compromiso cívico

una política integral de inmigración y asilo una política global con la autoridad suficiente para hacer cumplir a todos los países de la unión los compromisos que les correspondan no puede haber países insumisos la pertenencia a la unión europea conlleva estas obligaciones y el que no esté dispuesto a asumirlas debe ser sancionado pedimos

veintitrés de septiembre el problema de los refugiados y desplazados en todo el mundo es mucho más amplio

se calcula que en el mundo hay en estos momentos sesenta millónes de refugiados de los cuales la inmensa mayoría viven en precarias condiciones

en los campos de refugiados estamos hablando de acoger a unos doscientos cincuenta mil en una primera actuación que según cálculos que se hacen

pero es que en turquía o pakistán malviven

es que líbano con una población de unos cuatro millónes de habitantes acoge a uno millón de refugiados que en irán

más de medio millón de personas en cada uno de esos países está claro que es un problema global que requiere de compromisos globales estamos en un mundo globalizado

de mercancías y capitales pero nuestra gran asignatura pendiente es permitir el libre tránsito de las personas para los próximos años

será el de construir un modelo flexible de convivencia lo mismo que pensamos que es necesaria la implicación de europa consideramos imprescindible la implicación del gobierno de españa el gobierno español

le exigimos una actitud responsable y solidaria no la postura recelosa y cicatera que tuvo en un primer momento es una obligación

que nos correspondan los socialistas pensamos que se deberían aceptar sin reservas las propuestas de la unión también

como decía al principio de mi intervención nos congratulamos con la respuesta que se ha dado desde la ciudadanía y las instituciones más cercanas como son los ayuntamientos fue el ayuntamiento de eibar

y creo que se han dado pasos importantes para integrar euskadi en una verdadera red de ciudad de refugio con los dispositivos de acogida preparados el pasado dieciséis de septiembre el señor consejero toña nos daba cuenta una comisión de derechos humanos de las previsiones que tenían tanto de acogida en una primera fase como de los dispositivos dispuestos para el momento de acogida

nos dio cuenta de los recursos que se pondrán en marcha en materia escolar sanitaria

pensamos que estas actuaciones han de coordinarse también con los ayuntamientos y con las organizaciones no gubernamentales señorías la humanidad debe replantearse radicalmente

devolver la dignidad a millónes de personas debemos avanzar hacia un mundo que globalice las relaciones humanas

que caigan los muros y se construyan puentes los inmigrantes los refugiados son personas que merecen la oportunidad de conseguir una vida digna es responsabilidad de todos acabar con los naufragios en el mediterráneo es hora

actúen decididamente contra las mafias que están controlando gran parte de los flujos migratorios aprovechándose de quienes escapan del horror y que están provocando hechos tan deleznables como el que se ha descubierto hace dos días aquí mismo en hernani

que están viviendo estas personas necesitamos construir una sociedad mejor en la que todos nuestros niños y niñas respondan como aquel niño alemán

el consenso y la unanimidad son valores de referencia para quienes representando a los ciudadanos nos dedicamos a la actividad política

quimeras parlamentarias pero no siempre es así el martes en el congreso de los diputados no fue así antes de ayer los grupos parlamentarios acordaron una iniciativa para contribuir juntos a dar soluciones efectivas que contribuyeran a conformar un auténtico acuerdo de estado en materia

con ese ánimo debatieron una proposición no de ley del partido socialista y fueron capaces de llegar a un acuerdo unánime nadie se opuso con ese mismo ánimo afronta hoy el grupo popular vasco la cuestión

las personas refugiadas que aborda la proposición no de ley de bildu el martes los grupos parlamentarios se comprometían a excluir la materia

a incorporar el diálogo y el consenso en el proceso de toma de decisiones y procurar la máxima lealtad institucional

y la colaboración entre administraciones situando siempre en primer término las prioridades de la acogida e integración mientras ocurría esto tres refugiados se ocultaban en un camión frigorífico en hernani esa es la cruda realidad

que nos desborda a todos pero que tenemos obligación legal y ética

apelo al consenso también en el parlamento vasco reaccionar con diligencia responder con eficacia anticiparse a los acontecimientos en definitiva liderar es deseable en cualquier gobierno pero no tienen nada de malo que la sociedad civil sea quien apunte y manifieste como han hecho los vascos

nuestros ciudadanos los aquí representados por todos nosotros no esperan que nos enzarcemos en debates y declaraciones de superioridad moral ideológica

con este tema no son cientos de miles de personas huyendo del horror y de la guerra con avalanchas de refugiados que han puesto como nunca en tela de juicio la propia razón de ser de europa hace quince días tuvimos la oportunidad de conocer

las iniciativas que está impulsando el gobierno vasco junto con el resto de instituciones y las organizaciones sociales del tercer sector que trabajan en el ámbito de la acogida de las personas que solicitan asilo las organizaciones de cooperación al desarrollo

el consejero toña no escatimó explicaciones en la comisión partiendo de que la acogida a personas refugiadas es competencia de la administración general del estado se nos informó pormenorizadamente de todo aquello que compete al gobierno vasco y al conjunto de las administraciones públicas vascas en la gestión de esta crisis

y al rigor práctico por motivos de legalidad humanidad y responsabilidad sin partidismos ni paternalismos ni sensacionalismos ni propaganda ni demagogia la hoy proponente de la iniciativa que debatimos

y oídas las explicaciones cómo podíamos colaborar los grupos parlamentarios con el gobierno vasco pues bien llegando a consensos y desterrando este asunto de la confrontación política sería una excelente aportación de esta cámara legislativa pero

al consenso pero esa unanimidad podríamos hacerlo como lo hicieron nuestros co religionarios en el congreso de los diputados

ni siquiera el horizonte electoral de diciembre evitó esa buena y responsable disposición de todos seamos hoy consecuentes la enmienda que presenta mi grupo se remite a ese acuerdo ni más ni menos

tan solo dos días después no tendría ningún sentido nuestros ciudadanos consideran que acentuar las diferencias es algo inherente

es el juego político pero hay temas como los desplazamientos de miles de personas

buscan en nuestro continente seguridad libertad y derechos humanos que merecen una respuesta

la tragedia la desesperación el desarraigo

están apelando directamente a nuestras conciencias solo pensar que en ese éxodo masivo en torno a ocho mil niños se encuentran solos sin sus familias hace que aumente la angustia

a reaccionar sin demora los vascos solidarios y exigentes hemos conformado una opinión pública atenta a las iniciativas y las respuestas que desde euskadi se están adoptando nadie discute que la dimensión y derivadas del problema lo hagan difícil de acometer se necesitan medidas a todos los niveles desde el personal hasta el internacional pasando por el local

y esas medidas además no pueden ser algo únicamente espontáneo sino que son a corto a medio

en lo que al gobierno vasco compete directamente sí quisiera dar lectura a uno de los diez puntos que conforman el acuerdo suscrito por unanimidad el martes en el congreso de los diputados y al que hoy a través de la enmienda a la totalidad que defiendo quisiéramos

y quiero leerlo textualmente porque sí que nos compete en cosas muy concretas

hay que adaptar la respuesta dada a las necesidades de acogida integración de los refugiados a las nuevas cifras de llegadas y a las previsiones de la unión europea en materia de

bajo la coordinación del grupo interministerial creado al efecto

en el ámbito de sus competencias a través de la conferencia sectorial de inmigración y de acuerdo con la disposición adicional cuarta de la ley doce barra dos mil nueve de treinta de octubre reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria y en ese punto luego

cinco o seis en las que habla ya concretamente de temas sanitarios de escolarización de servicios sociales de integración

realizar y acometer una vez que los refugiados lleguen a estar entre nosotros todo lo que se acordó el martes por unanimidad en el congreso es importante pero este punto y todas sus concreciones es el que va a testar la capacidad de gestión y de liderazgo del gobierno vasco y es el que como parlamentarios vascos nos va a tocar controlar ya está en marcha lo sabemos por el consejero una comisión interdepartamental

interinstitucional que tiene que dar respuesta a esas necesidades y a esos derechos sanitarios sociales de educación de todas aquellas personas refugiadas que finalmente lleguen a euskadi es un trabajo con mayúsculas que nos dignifica a todos y nos reconcilia con nuestra condición de responsables públicos

sí gracias presidenta desgraciadamente en fin todo lo bueno que decidamos hacer

siendo importante no va a ser suficiente ni va a servir para resolver

es mejor escuchar y leer propuestas progresistas y respetuosas con los derechos humanos que opiniones cicateras y reaccionarias sobre la cuestión pero de nada servirán si no logramos que una unión europea realmente unida

que afectan a miles de personas y que actúe también con altura de miras y convicción inquebrantable allí donde se producen las causas que originan estos dramas las decisiones que tomemos aquí pueden ayudar pero las decisiones localistas locales

suficientes lo que se necesita es una política de inmigración y asilo europea común humanitaria respetuosa con los derechos humanos y con el derecho

europea mientras no lo logremos y suframos la insolidaridad y el nacionalismo de determinados estados no habrá solución hoy

estos días pasados se está demostrando que el nacionalismo cerril no solo es malo para europa es desastroso para europa para los europeos

estará bien pero no va a ser suficiente lo mismo ocurre con determinados pronunciamientos simbólicos como nombrar a determinadas

está bien y menos es nada e incluso pueden servir para cambiar determinadas medidas políticas que se han impulsado desde determinados países de nuestro entorno el nuestro

e incluso desde la propia unión europea en su conjunto pero como se ha dicho el problema es global y decisiones globales deben tomarse por cierto cabe subrayar para que a nadie se le olvide algo que ni siquiera deberíamos tener que decir pero que

vascos españoles y europeos los refugiados huyen de la miseria el hambre

la guerra y las vulneraciones de derechos humanos y que por lo tanto es obligación democrática ética política y legal de las instituciones democráticas vascas españolas y europeas hacer todo lo que sea necesario

toda la ayuda que necesitan y merecen en este sentido cabe señalar y denunciar que la actitud inicial del gobierno de españa fue por decirlo suavemente cicatera y perezosa y que solo la respuesta ejemplar de miles de ciudadanos vascos españoles y europeos ha logrado al menos en parte corregir

cuáles fueron los siete errores iniciales del gobierno de españa acusamos al gobierno de insensibilidad de miopía de falta de liderazgo

de antieuropeísmo y de improvisación no se trata de buscar la diferencia entre partidos políticos sin más se trata de hacer

al gobierno de turno en todo caso esperamos que efectivamente sobre todo la respuesta dada por miles de ciudadanos haya hecho variar las opiniones iniciales

de españa y que a partir de ahora pueda estar a la altura de las circunstancias podemos recordar nuestra propia historia vascos y españoles tuvieron que emigrar huyendo de la violencia la dictadura la miseria la persecución y la falta de libertades tal vez de este modo

inicialmente insensibles y que se pongan en el lugar de los refugiados que llaman a nuestra puerta en todo caso este es un problema

medidas políticas deben tomarse para solucionarlo así necesitamos ineludiblemente una europa unida más fuerte que avance hacia una unión política que destierre para siempre el nacionalismo egoísta miope e insolidario de determinados países y una política de inmigración y asilo europea común eficaz generosa respetuosa con los derechos humanos y que cumpla la legalidad internacional upyd ha presentado varias iniciativas en el parlamento europeo y en el congreso de los diputados así hemos defendido y defendemos además de lo anterior la aplicación de sanciones disuasorias contra los países miembro que no

o la puesta en marcha de un plan urgente para el refuerzo de la política exterior y de defensa integrada el comportamiento internacional libia y siria estuvo lleno de errores europa debe actuar con una sola voz en una ofensiva integral que incluya diplomacia cooperación y desarrollo

y exteriores también pedimos la plena aplicación de los artículos trece y catorce de la declaración universal de los derechos humanos en los que se recogen el derecho de toda persona a salir de cualquier país y a volver y el derecho a en caso de persecución

o la creación de un mecanismo permanente de reubicación que se active en situaciones de emergencia como la presente de un corredor humanitario que garantice el acceso de los refugiados a países seguros la reconversión del sistema de asilo dublín en una política de inmigración común

solo con terceros países que respeten los derechos de las personas solicitantes refugiadas o inmigrantes un estudio también urgente de impacto económico y social que se deriva del establecimiento de espacios de reasentamientos de refugiados dentro y fuera de la unión europea

y material propio y agilizar el proceso para la tramitación

y aumentar el presupuesto de las agencias o invertir en protocolos de buenas prácticas para la integración de los refugiados en los territorios que les acogen

de personas refugiadas con familiares en el extranjero cooperación de la unión europea y los estados con los actores sociales en la implantación ejecución y supervisión de las políticas de apoyo a la inmigración y tantas otras cosas que pueden y deben hacerse y obviamente actuar y tomar decisiones

sin resolver lo que ocurre allí no hay solución posible en fin son muchas cosas las que pueden y deben hacerse desde los ayuntamientos vascos desde el gobierno vasco desde el gobierno de españa y desde la unión europea nosotros en concreto estaremos atentos a ver qué es exactamente lo que hace el gobierno vasco la señora urrea citaba a saramago y está bien

en el congreso de los diputados cuando ayer mismo decía anteayer decía que se trata de defender y aplicar la idea de que el otro en el fondo es igual que yo aunque no sea igual en talento o en nacimiento desde luego sí lo es desde el punto de vista de que es un ser humano y también

que es europarlamentaria por upyd cuando decía que los personalismos no son una opción los intereses partidistas o electoralistas no son una opción la cueva envejecida y ensimismada no es una opción

y presionar a los colegas renuentes no es una opción las soluciones cortoplacistas las cifras ridículas y temporales para salvar la cara no son una opción

complicadas desactualizadas antes de producirse incluso el resultado más inoperante no son una opción los residuos de interés nacional la miopía localista la intolerable vulneración de principios rectores europeos no son una opción las alambradas

no son una opción hay que cambiar por lo tanto las políticas que se están aplicando desde distintos países europeos y hay que ir hacia una política común que resuelva este drama que evidentemente nos afecta a todos

son seres humanos los que estamos aquí también lo somos por lo tanto somos básicamente iguales eskerrik asko maneiro jauna

egin gauzak hemen eta sailburuak esaten zuen moduan en la gestión de esta crisis es tan importante el fundamento cívico como el rigor

por qué debemos de acoger a estas poblaciones refugiadas hor hiru printzipio

por un principio de humanidad tenemos el deber humano y humanitario de solidaridad esto significa prestar auxilio a quien se encuentra en una situación de padecimiento necesidad o emergencia bigarrenik por un principio de responsabilidad tenemos el deber de asumir

y los derechos humanos y así como el compromiso institucional político y social derivado de la misma

esaten zuen ere bai por un principio de legalidad tenemos el deber de cumplir con el derecho internacional

el artículo catorce de la declaración de derechos humanos y el artículo dieciocho de la carta de derechos fundamentales de la unión europea

rechazamos cualquier forma de utilización demagógica sensacionalista propagandística

baita con rigor lo que implica buscar alternativas ágiles eficientes viables

de que son necesarias respuestas de permanencia a medio y

eta baita desde una visión de globalidad actuando sobre las consecuencias aquí en euskadi

esa declaración institucional que propuso el partido nacionalista vasco tras nuestra

desde luego ya lo dijimos en la junta de portavoces y lo volvemos a repetir aquí no íbamos a aprobar una declaración institucional como no hemos entrado a esta enmienda transaccional con una propuesta que aborda las consecuencias de lo que está sucediendo pero no

algo parcial no encajaba precisamente dentro de nuestros principios

ustedes hacían referencia al valor humano de los refugiados a no faltar

la dignidad y yo les pregunto qué pasa con los centros de internamiento de extranjeros que si les recuerdo además el partido socialista y el partido popular votaron favorablemente para aprobar no solo elcentro de internamiento para extranjero sino que además pasaran de seis

estos campos de concentración donde se tienen retenidas a las personas que supuestamente son migrantes porque se les da una orden de expulsión pero que son potenciales refugiadas y solicitantes de asilo dónde están en esos momentos también

de hacerlo antes de presentar esta proposición no de ley en un pleno adecuado para ello

pero es que señorías además ustedes se contradicen porque en una de las

en uno de los puntos de la enmienda transaccional hablan de cuanto antes un plan de actuación efectivamente estamos de acuerdo y por qué no han aceptado

antes exigir al gobierno vasco un plan de actuación en esta materia el partido popular habla del acuerdo unánime el martes en el congreso efectivamente este grupo en el congreso de los diputados votó a favor y les voy a decir por qué votó a favor

le requirieron a este grupo parlamentario que hubiese unanimidad en esta propuesta que trasladamos previamente a ellos para que la analizaran

porque hay un punto sobre todo en el que hace referencia a la legislación

desde que se aprobó el reglamento doce barra dos mil nueve reguladora del derecho al asilo y la protección tanto el partido socialista como el partido popular no han hecho absolutamente nada para trasponer estas directivas o aprobar esta ley

y es que además nos hablaba efectivamente los tres refugiados kurdo iraquíes

rompiendo diferencias políticas es necesario hacer referencia

precisamente hablaba no hablaba ni siquiera de personas refugiadas un portavoz de su partido hablaba de yihadistas directamente

basta con darse un paseo por las vallas de ceuta y melilla para ver la vulneración sistemática de derechos humanos que se está viendo allí lo hemos comprobado en una comisión de derechos humanos de este parlamento también son responsable de las quince muertes de las personas refugiadas en la playa de tarajal y por tanto es que desde luego cuando hablamos de ir todos a una y de manera unánime

no puede haber hipocresía por delante hay que llamar a las cosas por su nombre y en ese sentido hablando también en coherencias políticas desde luego mostramos en la comisión mostramos disposición para colaborar con el consejero porque nos parece que era en lo que nos teníamos que centrar precisamente

y comentamos en torno a respaldar esta propuesta que se iba a llevar a cabo y que además íbamos a estar vigilantes con ello

pero no hubo en este caso la voluntad porque se quería ir más allá y para nosotras era un punto rojo

de sus consecuencias también además nos parecía muy importante y a pesar de que quisieron evitar traer este tema a debate porque tenemos que hacer un debate político porque para eso estamos en esta cámara para abordar no solo las consecuencias y para decirnos los unos a los otros pobres refugiados que vienen y hay que acogerles

y también en esta comunidad autónoma señorías porque estamos hablando por ejemplo de la coherencia en las políticas públicas cuando se habla además de que se van a destinar ayudas a siria nos gustaría saber en relación exactamente

y es que por ejemplo mientras destinamos recursos

israel como socio preferente del que literalmente hay mucho que aprender por tanto

destacar así mismo es que no solo tenemos que abrir los ojos con las personas que

en el limbo burocrático en el limbo jurídico pendientes

sin plenitud de derechos y acceso a servicios y todos los sabemos

que también es muy importante fijarnos en esas personas refugiadas que están viviendo en esta comunidad autónoma no nos podemos excusar en esa falta de competencia en materia de política migratoria y asilo

desde luego tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer una acogida en condiciones dignas a las personas que van a venir que han llegado y que

y usted nos ha venido aquí como es habitual a darnos ideología su ideología

que ideología es la interpretación del mundo y todos tenemos una ideología

es que algunos admitimos la crítica

porque son más abiertas y otros tienen una ideología más cerrada como la suya en la que

no tiene ningún cauce para el debate o la crítica pero hay más nosotros los y las socialistas

de una importante carga de mentalidad que es un sistema abierto

que ayudan a la gestión de los problemas que tiene el mundo eso es lo que queríamos plantear aquí porque creemos que este asunto este problema lo que requiere es más mentalidad que ideología

que debate ideológico lo que requiere es apoyo de todos y no confrontación y usted en este caso no aporta nada no se va a sumar a pretendido llevarnos a un debate

que mi ideología sobre el asunto no es la misma que la de los nacionalistas o de los populares o de upyd

la gestión del problema nuestra mentalidad es abierta la ideología nos la dejamos para apoyar en nuestra mentalidad apoyar nuestra gestión de este problema y esto señora urrea yo creo que es

deberíamos haber hecho lo que se debería haber hecho ya con la declaración institucional que nosotros le reclamábamos ha venido hacer ideología una ideología cerrada una interpretación del mundo que es el suyo

me alegro de haber llegado a una enmienda transaccional lamento que no haya podido ser por unanimidad el cuarto punto hace referencia expresamente a todo bueno al acuerdo al que se llegó en el congreso

nos quedamos satisfechos no hemos suscrito todos los puntos pero sí quisiera referirme al quinto y último

de la enmienda porque es el que hace el que expresamente se circunscribe a lo que es la acción del gobierno vasco el resto al final está muy bien pero son

instituciones en las que no tenemos capacidad directa de influir me centro en este punto porque ya sabemos que el gobierno vasco se ha puesto

interinstitucional también sabemos que el gobierno vasco

sectorial de migraciones en el ámbito del ministerio de empleo y seguridad social

operativo mucho más concreto tangible donde están integrados los directores generales de todas las comunidades autónomas

hacer algo importante y urgente que es un mapa de recursos para dar respuesta

el objetivo último de todos que es la verdadera integración entre nosotros el gobierno vasco los grupos parlamentarios lo que tenemos que trabajar es para

que no es poca labor y así poder integrar a los refugiados que vayamos a acoger

para reproducir sesiones y debates con más o menos que tienen lugar en otras cámaras lo hacemos constantemente con todos los temas no pero no

que adaptar y poner en marcha hay que tener en cuenta que esa comisión interdepartamental

salud seguridad educación hacienda y finanzas empleo y políticas sociales eso nos da

se van a tener que implementar un sin fin de políticas e iniciativas de manera coordinada y eficaz rápida diligente y eso no me parece poco menester para que tratemos aquí

como parlamentarios vascos ya digo que eso va a ser el día a día

de hoy para mañana sino también a medio plazo seis meses un año esto es algo va a requerir medidas estructurales desde luego como europeos españoles o ciudadanos del mundo podemos tener nuestra opinión criterio y capacidad de crítica de lo que está

pero también yo creo que es lo fundamental tenemos unos deberes y unas obligaciones ya y por eso como vascos

que dependen de nosotros de nuestra gestión dependen de nuestros recursos dependen de nuestros presupuestos de nuestros funcionarios de nuestro impulso político de nuestros

popular lo que haremos es contribuir a favorecer a coordinar y a hacerlo desde la lealtad y la seriedad controlando también la acción del gobierno se han leído citas de saramago y de martínez goriarrán ambos dos podrías citarse porque

filósofo muy acostumbrado a pensar por cierto pero yo me acuerdo un día como hoy de stéphan hessel que es una de las cosas más

cuando tuve ocasión de charlar con él

el último superviviente de la declaración de los derechos

hace rica a una sociedad no son los recursos económicos sino la solidaridad gracias eskerrik asko ruiz andrea

bai eskerrik asko presidente andrea señora urrea el gobierno vasco

el gobierno vasco ya estaba actuando eta nik ez dizut aitu

no vengo aquí a frivolizar sobre este tema que meparece muy serio eta nire ustez zure legez besteko proposamenak

seriedad mesura y discreción rechazando cualquier forma de utilización demagógica sensacionalista propagandística partidista o paternalista del drama y de sus víctimas zuk guztiz